nos hemos finalmente abstenido a la toma en consideración d esta proposición de ley porque nos mostramos críticos con el contenido

y con la forma de proponerlo al fin y al cabo y por resumir se propone modificar una ley ante el hecho cierto de que los municipios

o bien por irresponsabilidad o bien porque no han tenido o no tienen capacidad suficiente lo que evidentemente nos hace preguntarnos en voz alta por qué no tienen capacidad suficiente para cumplir la ley qué es lo que ha fallado es que la ley es mala es que los municipios no quieren cumplir la ley es que no tienen capacidad suficiente es un cúmulo de problemas qué es exactamente lo que es yo creo que es esto precisamente

según la exposición de motivos el gran coste económico que conlleva la redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico y la falta de recursos para costearlos así como la larga duración de los procedimientos de revisión del planeamiento son serios obstáculos a los que han de hacer frente los municipios para poder cumplir el plazo en cuestión tanto el gran coste económico que conlleva la redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico como la falta de recursos para costearlos

resolverse a través de un proceso amplio y ambicioso de fusión de municipios al menos en bastantes casos podría resolverse este problema

desde hace años en solitario los ayuntamientos grandes

al parecer según se nos dice es más una cuestión de enfrentarse a un proceso y tedioso mientras que los pequeños tienen problemas de financiación habrá que resolver por lo tanto estos asuntos en cuestión en lugar de proponer chapuzas o trampas políticas o jurídicas consideramos que

por parte del consejero para ampliar o disminuir el plazo ya digo que es una especie de chapuza una especie de trampa para cumplir indefinidamente la ley sin cumplirla realmente nunca y en todo caso demuestra que los proponentes de esta iniciativa creen que pueden pasar nuevamente

la legalidad vigente o las exigencias establecidas en la ley sobre lo que se propone evidentemente se plantean varias incógnitas cuáles serán los argumentos objetivos que la consejera o el consejero competente en materia de urbanismo considerará necesario para la ampliación o disminución de los plazos

y se incumpla de nuevo la ley exactamente cuáles o lo que se pretende realmente es que se cumpla la ley sin realmente cumplirla nunca

o se impulsarán nuevas prórrogas legales o del consejero competente cuáles son concretas y concisas que ustedes plantean nosotros en todo caso somos partidarios de exigir a los municipios que cumplan la ley y que

se analice a fondo las razones por las cuáles no puede cumplirse es irresponsabilidad es dejación es incapacidad es que es una mala ley

a qué se debe esa incapacidad podría resolverse este hecho si lleváramos a cabo un proceso de fusión de municipios del tipo de los que ya se han llevado a cabo

podría resolverse este problema de algún otro modo en fin de qué modo en todo caso en nuestra opinión es mala práctica esto de modificar las leyes

es modificar una ley porque se ha visto que no se cumple sobre todo si estas modificaciones legales son simples parches y no se va al fondo de la cuestión por tanto no hay un verdadero análisis de por qué no se ha adaptado no se ha cumplido esta legislación en ocho años y sin este análisis y sin aplicar las soluciones que se necesitan podemos encontrarnos en la misma situación transcurridos otros quince años quizá por eso se incluye ahora la discrecionalidad del consejero o la consejera para ampliar

en un país donde prevalecen las chapuzas políticas y las improvisaciones no estamos ante otra chapuza política y otra improvisación teniendo en cuenta que el plazo finaliza a penas dentro de tres meses para que los municipios adecuen sus planes generales y normas subsidiarias a la ley

improvisación ante otra nueva chapuza política por qué no se trajo esta ley antes qué hizo el anterior gobierno qué ha hecho
este gobierno maneiro jauna amaitzen joan mesedez de cualquier manera y termino nos hemos abstenido porque efectivamente este es un problema

porque de no hacerlo los ciudadanos serían nuevamente las víctimas y los perjudicados y a partir de ahí evidentemente presentaremos nuestras enmiendas